ez bazen proposatzen hona hemen bere hitzak en este caso estamos ante una fiesta que divide se produjo división hace tres años cuando se aprobó la ley

se produciría división también en el caso de promover su derogación este gobierno no rehuye el debate de buscar una fecha adecuada pero sí estamos de acuerdo en el diagnóstico en que las fechas están para unir en que las fechas son motivo de celebración

que es lo que usted está pidiendo el gobierno en las próximas semanas va aprobar el calendario del año dos mil catorce porque tiene obligación de hacerlo y en ese decreto

porque no tenemos tiempo material en estos momentos para modificar esa ley pero por algo más importante

con derogar la ley porque lo que este parlamento debe hacer y por lo que este gobierno debe abogar es por la búsqueda de un consenso mayoritario y un consenso mayor que el que tuvo esa ley

y porque en eso es en lo que nos debiéramos empeñar en este sentido hemos trasladado que no nos gusta la fecha que no compartimos la fecha y hemos dado razones

cuál cree que es la fecha que merece ser celebrada por esta comunidad insisto

esa fecha de coger ese guante y de trasladar a la sociedad que somos capaces de llegar a acuerdos

lehendakari obviamente votaremos en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del grupo nacionalistas vascos que propone derogar

a la declaración del veinticinco de octubre como día del país vasco ya lo defendió eh bildu hace unas semanas y es coherente con su postura no cree

quiere la conformación de la gran euskal herria y quiere romper nuestros vínculos políticos con el resto de españa desprecia nuestro marco de convivencia

a la sociedad vasca quiere sacarnos de españa y quiere sacarnos de europa a partir de ahí

veinticinco de octubre deje de ser el día de euskadi porque fue ese día cuando se aprobó

aquello que junto con la constitución española garantiza nuestra convivencia y nos une al resto de españa

recogió el testigo de eh bildu y decidió hacer seguidismo de los planteamientos rupturistas y disgregadores de eh bildu de ahí surge esta proposición de ley

es una lucha fraticida entre las dos corrientes del nacionalismo vasco la que quiere la independencia hoy y la que quiere la independencia mañana ambas obtusas insolidarias rupturistas y antieuropeas

adoptada por una mayoría parlamentaria distinta a la suya no fue obviamente una imposición fue una decisión legítima tomada por este parlamento

una imposición quiero insistir en el cambio de criterio del partido nacionalista vasco el consejero aburto en una primera interpelación sobre el asunto afirmaba sobre la posibilidad de derogar la ley que hoy se plantea derogar lo siguiente

añadió expresamente que se produciría división también en el caso de promover su derogación bien

promueve su derogación y por lo tanto provoca división el señor consejero dirigiéndose al señor

no cree usted que algunos debates a los que venimos asistiendo en esta cámara tienen poco que ver con las preocupaciones de la ciudadanía añadió

representante del gobierno este debate genera nuevamente división traslada a la sociedad un mensaje de conflicto da la impresión de que no le resolvemos los problemas sino que se los creamos el consejero mostró reiteradamente su desacuerdo con la ley es cierto pero insistió en que no creemos que sea el debate de reabrir de cara al año dos mil catorce

con las necesidades que tiene la sociedad porque hacer un debate público para derogar esa ley llevaría solamente a evidenciar nuevamente la diferencia y el desacuerdo

hizo referencia al programa legislativo del gobierno y afirmó que en ese programa legislativo este gobierno

un proyecto de ley que modifique la ley dos barra dos mil diez y anunció

de dos mil catorce será festivo nuevamente en el país vasco por tanto en nuestra opinión es obvio que el partido nacionalista vasco se ha dejado arrastrar

upyd repetimos los argumentos ya expuestos incluso el pasado día cuatro de diciembre del año dos mil nueve

aunque proponemos reformarlo del mismo modo que proponemos también reformar profundamente la constitución española pensamos que una cosa no quita la otra porque somos profundamente respetuosos con los marcos jurídicos establecidos democráticamente aunque propongamos cambiarlos somos respetuosos con las normas básicas que garantizan nuestra convivencia aunque pretendamos modificarlas y hacerlo obviamente a través de los mecanismos legales establecidos

la mayoría de los vascos y que nos permite convivir juntos y unidos al resto de españa por ello

fuera día festivo en el país vasco y por ello upyd defiende que el día veinticinco de octubre siga siendo festivo en el país vasco por ello

del año dos mil nueve y rechazamos la propuesta de hoy del grupo nacionalistas vascos porque el estatuto

jurídico actualmente vigente y nuestro marco de convivencia porque entendemos el valor del estatuto independientemente de que pretendamos reformarlo se trata de nuestro actual marco jurídico y nuestro marco de convivencia aquello que nos permite vivir todos juntos y en nuestra opinión insisto esto es lo fundamental del asunto es ciertamente

la representada por el nacionalismo la que aprobara aquella iniciativa es ciertamente llamativo que el nacionalismo haya preferido siempre festejar sus fiestas

objetivamente representa a todos los ciudadanos de euskadi sin ningún tipo de exclusión en fin llama la atención que quienes han estado gobernando casi siempre euskadi

fueran los que se opusieran en su momento a esta iniciativa y sean ahora los que arrastrados por eh bildu decidan derogar esta ley pero la explicación

el nacionalismo ha considerado siempre que el marco jurídico que nos habilita como sujeto político dentro del estado al que pertenecemos no es más que un paso previo y un instrumento

votaremos en contra de la toma en consideración dicho esto

quizás no sea tan importante que se celebre o no el día del estatuto de gernika quizás efectivamente no sea tan importante

pero en fin observando cuáles son los problemas que tiene euskadi ya digo que quizás no sea tan importante celebrar una determinada fiesta

cuáles son los problemas fundamentales que tiene euskadi efectivamente la crisis económica el paro los desahucios el descrédito de la política

la necesidad de aprobar nuevas leyes la necesidad de reformar la ley de territorios históricos la necesidad de reformar el entramado institucional vasco el mantenimiento del estado del bienestar esto es realmente lo importante en euskadi y lo que realmente importan al conjunto de los ciudadanos y esto es por lo tanto en lo que

y todos los grupos deberíamos centrarnos en resolver los problemas fundamentales que tienen los ciudadanos en lugar de debatir sobre cuestiones que

también quería obviamente decirlo por lo tanto con este panorama

económica de graves problemas que sufren los ciudadanos vascos lo más grave no es que el gobierno vasco o el grupo nacionalistas vascos propongan derogar una determinada ley para que deje de ser festivo el día del estatuto sino

no apruebe ninguna ley y no impulse las reformar que euskadi necesita y no trate de resolver

en esto debería centrarse el gobierno en esto debería centrarse cada uno de los grupos parlamentarios y en esto debería centrarse el grupo nacionalistas vascos también que apoya al gobierno en lugar de impulsar debates que no importan a nadie

leyes que en su momento fueron importantes y que fueron aprobadas por una mayoría en este parlamento lo que tiene que hacer es gobernar lo que tiene que hacer es tratar de resolver los problemas fundamentales que tiene euskadi insisto que los problemas fundamentales son de empresas el paro la crisis económica el desempleo la falta de actividad esto es lo fundamental y esto es lo que debería hacer el gobierno impulsar

las leyes actuales que sean necesarias en lugar de proponer la derogación de una determinada ley que en nuestra opinión fue un avance fundamental para euskadi en esto debería centrarse no solamente el grupo nacionalistas vascos
y especialmente este gobierno vasco gracias eskerrik asko maneiro jauna

andrea mila esker lehendakari jauna legebiltzarkideok muy buenos días a todos

en esta noria vasca que se mueve permanentemente pero que parece como las norias no avanzar lo que sí parece claro también es que

hoy confirman ustedes la escenificación clara de que no apuestan ni por el entendimiento ni por el acuerdo en euskadi

confirman hoy ustedes que les gusta más la confrontación

la celebración del pacto que permite que hoy ustedes gobiernen y que todos

sentados o podamos estar sentados en este parlamento consuman el partido nacionalista vasco consuma como primera iniciativa parlamentaria el portazo al entendimiento el portazo a la puesta en valor de lo que nos une por encima

comienzan lalegislatura seis meses más tarde con un rotundo no pero a diferencia de lo que se ha dicho aquí

de un día estamos ante algo más importante quizás ustedes no lo han dicho

hoy consuman su no a la conmemoración del más importante y trascendente acuerdo político entre vascos de nuestra historia contemporánea eso es lo que hoy hacemos y nuestro país no está sobrado precisamente de grandes acuerdos políticos

no podemos presumir los vascos de tener una historia de entendimiento político tampoco en nuestra historia reciente tampoco en nuestra historia más contemporánea la política vasca bien azotada por la violencia o por la intransigencia vapuleada por la división

solo ha encontrado un gran punto de entendimiento en nuestra historia reciente que es el estatuto de autonomía de mil novecientos setenta y nueve los grande acuerdos políticos entre diferentes

están sustentados siempre en grandes renuncias

en la talla de quienes hicieron posible a través de renuncias parciales acuerdos globales pero eso al partido nacionalista vasco parece que ya no le gusta

dotada de legitimidad democrática representativa y garante de nuestra pluralidad y diversidad hoy recibe un portazo un gran no por parte del partido nacionalista vasco una vez más y paradójicamente quienes más han disfrutado del régimen de libertades definido por el estatuto de autonomía que es el pnv paradójicamente

por el estatuto de autonomía que es el partido nacionalista vasco es precisamente quien más deslealtad demuestra a la palabra dada

la cultura del pacto ustedes el partido nacionalista vasco se alejan cada vez más de la euskadi real de esta de la euskadi global

la que avanza a pesar de ensoñaciones se alejan de una euskadi de una nueva euskadi conectada con un mundo en cambio

de la euskadi no amarrada a debates patrioteros aburridos y caducos de la euskadi que se distancia de esos políticos incapaces de asumir y de asimilar los nuevos tiempos tiempos desde luego más cercanos a la euskadi estatutaria a esa del pacto

y de ensoñaciones místicas y no deja de sorprender que usted señor lehendakari y su partido denigren el marco jurídico permanentemente denigren el marco jurídico que les permite gobernar que le ha permitido gobernar casi ininterrumpidamente durante treinta años

es la euskadi del estatuto la euskadi a partir de mil novecientos setenta y nueve

existen como ya dije variadas confusas hasta disparatadas formas de entender lo vasco

sobre lo que somos eso es obvio pero solo hay algo que nos une a todos y ese algo es el estatuto de autonomía del que emana este parlamento

es este entramado institucional que solo ha existido desde mil novecientos setenta y nueve

en definitiva señorías nos unen el acuerdo nos unen las renuncias

confirman que prefieren la división al acuerdo hoy ustedes confirman que no celebran el entendimiento

hoy ustedes confirman que para el partido nacionalista vasco la euskadi de la división la que pone el acento en lo que nos separa

de un futuro de acuerdo y de entendimiento y eso es verdaderamente preocupante ustedes hoy

con ese misticismo nostálgico y plagado de falsificaciones y ensoñaciones

al siglo diecinueve y que nos lastra a los vascos para competir con garantías en el siglo veintiuno para ustedes lo que entre todos hemos acordado no tiene ningún valor es algo coyuntural por eso no merece ni su respeto ni su cuidado como mucho un disimulado desprecio mientras funcione y les beneficie

su misión histórica es sustituir los acuerdos

y el no lograrlo es esgrimido como prueba patente del ataque del que dicen ser objeto y así continuamente alimentando permanentemente la noria vasca

y mientras medio mundo celebra la ruptura de barreras mientras los ciudadanos buscan puntos de encuentro aquí ustedes

de lo que pudo haber sido siguen mirando al retrovisor permanentemente mirando el retrovisor y quieren además obligarnos al conjunto de los vascos a que miremos permanentemente también hacia atrás

hoy ustedes y bildu van a vencer es cierto hoy el pnv y bildu va a ganar eso es verdad van a despreciar conjuntamente el entendimiento y además lo van hacer ustedes el partido nacionalista vasco de la mano

el entendimiento entre vascos eso es lo que va hacer hoy el partido nacionalista vasco hoy el pnv de la mano de bildu

no solo nos va a impedir celebrar el entendimiento la euskadi moderna que fue capaz de superar una negra etapa lo que es peor es que hoy el pnv junto a bildu celebran y van a celebrar ustedes hoy su particular fiesta de la ruptura y señor urizar a ustedes ustedes y el pnv sí coinciden

hay una cosa que les separa mientras ustedes ansían una euskadi

estos señores ansían una euskadi endogámica pero el objetivo es el mismo una euskadi aislada

cada vez más abierto ustedes comparten una euskadi cada vez más encerrada en sí misma

y no vamos a sumarnos a su portazo con este partido popular con este partido popular

no cuenten con nosotros para separar a los vascos y cada vez que ustedes

como hoy nosotros estaremos poniendo en valor el sí nosotros estaremos poniendo en valor el acuerdo el entendimiento en euskadi y entre vascos porque si en todas las circunstancias y esto probablemente es una manera particular de entender la política señor egibar

la búsqueda del entendimiento debe de guiar la acción política la búsqueda del acuerdo la ruptura de barreras debe de ser una guía en el ejercicio permanente de la política

de tanta incertidumbre de tanto descrédito en un momento en el que los ciudadanos buscan referencias estables los políticos no podemos enredarnos en debates de políticos

y en profundizar en nuestras diferencias tenemos que buscar a través de las renuncias parciales acuerdos globales ustedes se alejan del acuerdo se alejan del acuerdo una vez más rompen espacios de entendimiento y de acuerdo entre vascos y ahí desde luego

presidenta bueno hoy hemos asistido aquí por parte del

de malabarismo político que consiste en decir hoy como la propuesta la trae el pnv se va a hacer y se va a poner en marcha un ejercicio legítimo

y sin embargo anteriormente cuando otra mayoría distinta aprobó la constitución de un día de euskadi

pero si esto es una decisión legítima que lo es porque hay una determinada mayoría

y si no tendremos que convenir que esto también es una imposición si usted me dice que lo otro lo fue y esto lo hacemos además enmarcado en una especie

de declaraciones en las que un día el señor aburto nos dice

derogar la festividad y pocos días después el señor egibar previa presentación de una moción por parte de bildu nos dice que no

que no solo es inconveniente sino que no vale la pena colocar otra fiesta pocos días después el lehendakari nos da una fecha y usted nos dice no esto es un ejercicio

y después ya el gobierno decidirá mediante decreto qué día sustituye esta fiesta y por lo visto para usted es mucho más democrático que eso se haga mediante decreto del gobierno

a mí siempre me ha parecido que una decisión adoptada por la mayoría de un parlamento es tan plenamente democrática y en cualquier caso al menos igual que la que emana de la legitimidad de un decreto del gobierno pero desde luego mucho más representativa por lo tanto creo que aquí

de vodevil por parte de ustedes y por parte del gobierno en el que cada semana parece que se ensaya un número nuevo a ver cuál es el que acertamos que encaja con la ciudadanía y además parece bastante revelador que el mismo día que este gobierno

a una proposición del pnv por cierto con una celeridad y diligencia digna de mejor causa

decía no a otra proposición que defendía una prioridad tan clara para este país como garantizar el acceso

todo el mismo día este es un gobierno que tiene mucha prisa parece ser en eliminar la fiesta del veinticinco de octubre pero ninguna para resolver problemas graves que aquejan a la ciudadanía y además por cierto lo hace con muy poca autoridad incluso entre los suyos porque el mismo ejecutivo que nos dice un día

improcedente porque divide a la ciudadanía y no es el absoluto prioritario no voy a volver a leer

aburto ese mismo gobierno es el que decide darle máxima prioridad ante el golpe de mano que su propio grupo parlamentario le ha puesto encima de la mesa pocos días después en fin la coherencia y la firmeza en los principios no parece que sea la seña de identidad que caracteriza a este gobierno

según de dónde sople el viento un día nos habla del derecho a decidir de los vascos y al siguiente nos dice también que hay que esperar a lo que diga el gobierno de madrid

sobre temas que nos competen en exclusiva como es la ley municipal o la ley de vivienda un día se muestra ferviente defensor de la constitución como fundamento del concierto

porque le interesa pillar cacho en los caladeros electorales de bildu o evitar que estos lo hagan en el suyo porque esta y no otra razón es la de que el consejero de empleo nos diga una cosa en este parlamento y a los pocos días en esta misma cámara el señor egibar nos diga justo

y esta es otra característica de este gobierno que se preocupa mucho más parece ser por defender sus cuotas de poder que por resolver los problemas

y entre las prioridades del nacionalismo y las de la inmensa mayoría

está optando por las prioridades del nacionalismo y nosotros es evidente que vamos a rechazar la toma en consideración de esta proposición porque sinceramente seguimos sin entender por qué un gobierno que tiene su base en este estatuto de autonomía se opone a celebrar por ley el aniversario del referéndum estatutario como día de euskadi

nos digan ahora que el día de euskadi hay que derogarlo porque es una fiesta que divide a los vascos porque el pacto estatutario nos une mucho más que la celebración del aberri eguna entiendo que también es una celebración de vascos pero solo de una parte de los vascos y que además divide a los propios nacionalistas que lo celebran

en una institución estatutaria como es este parlamento estamos todas las fuerzas políticas de euskadi

solo están las diferentes parroquias del nacionalismo y hoy hemos tenido aquí un ejemplo de cómo se mueve este mundo hoy se tiran ustedes los trastos a la cabeza para al final acabar apoyando

un debate de nacionalistas sobre cosas de nacionalistas

y hagan el teatrillo no entendemos que nadie en este país y menos si se llama patriota pueda oponerse el día en que después de cuarenta años de dictadura

el autogobierno que nos arrebató la dictadura franquista y con el autogobierno sus competencias como el concierto económico y todos los instrumentos que de él se derivan no entendemos por qué el veinticinco de octubre no se pueden celebrar los avances que se han construido

con este estatuto en la mano por qué no podemos celebrar el hecho de disfrutar al menos de momento

de unas políticas de protección social que son la envidia del resto de españa de unas políticas de innovación y de apoyo al tejido productivo como las que hemos podido generar entre todos para poner en marcha a lo largo de estos años una estructura económica potente

una policía propia considerada por cierto una especie de grupo de zipayos porque ni les van a apoyar hoy y de unos medios públicos de comunicación y de un apoyo al euskera como jamás se ha conocido

cuando han fracasado todos los intentos de quienes durante tantos años intentaron combatir precisamente este estatuto y justamente ahora cuando han perdido esa batalla es el propio partido que apoya al gobierno vasco el que deslegitima al estatuto a las instituciones y hace causa común vaya por dios con aquellos que lo estuvieron combatiendo hasta antesdeayer

no queremos incurrir en esa irresponsabilidad vamos a querer seguir siendo leales con este país y por eso defendemos que se siga celebrando el día del estatuto seguiremos reiterando su vigencia

entre vascos independientemente de las diferencias o del mayor o menor alejamiento que cada uno tengamos hacía él y seguiremos defendiendo el consenso político y social que el estatuto ha ido haciendo posible a lo largo de más de treinta años seguiremos también comprometidos con la defensa

de nuestro marco de autogobierno que puede seguir rindiendo frutos en el futuro y lo debe de hacer como lo ha hecho en el pasado para caminar hacía una euskadi

solidaria y de progreso por eso queremos que siga siendo el veinticinco de octubre una fecha a celebrar por todos los vascos cuando más necesaria es la unidad de partidos para hacer

a la crisis llamamientos que hace por cierto reiteradamente

el nacionalismo gobernante nos viene a someter a un debate artificial que no parece ser el que les quite el sueños a los ciudadanos vascos en este momento con una pretensión

dividir a la sociedad vasca por motivos identitarios y simbólicos cuando más necesario es trabajar a favor de objetivos de ciudadanía compartidos

que la experiencia demuestra que si han servido para algo ha sido siempre para separarnos y quieren acabar con el día de euskadi

al día de la marmota al de los viejos enfrentamiento identitarios

y señores de bildu el tiempo no pasa en balde como no pasa en balde el cambio político que se ha introducido en este país

a este parlamento no es otra cosa que una farsa destinada a ocultar

y la incapacidad de este gobierno para abordarlos al final es una propuesta para adormecer a los vascos con emociones patrióticas pero al final sin dar soluciones de verdad a los problemas

de hace unos días la verdadera mayoría sindical de este país la que trabaja en defensa de los convenios colectivos amenazados y de los derechos laborales de más de trescientos mil trabajadores en euskadi

en el problema y dejar de ser un espectador pasivo pero este gobierno el mismo

está muy preocupado por derogar el día de la festividad del estatuto en fin nosotros no vamos a caer en ese juego y por eso no vamos a apoyar

batzuk eta besteek egiten ditugun balorazioak las valoraciones que unos y otros podamos hacer de la fiesta del estatuto pero

haciendo esta incursión en la legitimidad o no de las decisiones de unos y otros

no señor yo he dicho que nosotros vamos a derogar una imposición

decimos que no estaba la mayoría social y política de este país en este parlamento

y portavoces del partido socialista y partido popular por qué regla de tres pasamos de un parlamento

el año dos mil diez que tiene una determinada composición por qué

de tener ustedes la mayoría absoluta que la tenían pasan a sumar veintisiete de treinta y nueve

y por qué quienes en aquel momento pnv cuatro de aralar uno de ea y otro de ezker anitza que sumábamos treinta y seis pasamos a cuarenta y ocho por qué regla de tres

que ustedes con aquella mayoría desde luego no buscaron el consenso del partido nacionalista vasco porque el cambio democrático les obligaba a imponer la fecha legalmente evidentemente con los votos necesarios pero qué es lo que estaban intentando hacer y lo hicieron

en la intervención del señor egiguren en aquel momento

argumentación suficiente como para saber exactamente incluso en opinión del partido socialista qué pensaban del estatuto hablando de las singularidades del estatuto eso es una propina una propina añadida que tenéis en vuestro estatuto denbora bukatu da yo en aquel momento recordaba

portavoz de un determinado debate sobre el aberri eguna y

está en que sumando en este momento cuarenta y ocho derogamos una ley

derogamos una imposición y pudiendo no ya imponer establecer otra fecha

no lo hacemos primero porque respetamos el estatuto y porque respetamos también las mayorías y otras sensibilidades que puedan

contemplarse en esta cámara no imponemos

una imposición y lo demás dígame ustedes en este momento si cuarenta y ocho de setenta y cinco parlamentarios o sea el sesenta y cuatro por ciento de la cámara

cuando en el fondo de la cuestión upyd no cree en el estatuto quiere anular el concierto económico quiere que desaparezcan instituciones vascas el partido popular dice que nos hemos instalado en el no no

alianza popular al estatuto no no no alianza popular votó no y el partido socialista entiende que el estatuto

una propina por lo tanto a partir de ahí la mayoría de cuarenta y ocho hoy deroga una ley deroga una imposición

y no establecemos ni imponemos ninguna otra fecha

bien es cierto y que hoy pretendían derogar una imposición y usted enredaba su discurso en aritméticas en números

no desvíen la atención esto es algo mucho más importante de lo que estamos hablando estamos hablando

estamos hablando en el fondo de una forma de entender euskadi estamos hablando en el fondo

en una sociedad plural y compleja como la nuestra y estamos hablando en definitiva

para afrontar un futuro que sea mejor del que ha sido el pasado

a través de renuncias y a través de acuerdos encontrar un punto de entendimiento inédito en la historia de euskadi que fue el estatuto de autonomía

un punto de encuentro también en base a renuncias particulares claro que sí eso es democracia eso es entendimiento eso es política con mayúsculas y de lo que estamos hablando es que menospreciar ese acuerdo y ese entendimiento afrontar y demostrar una manera de entender euskadi que no nos posiciona desde luego de una manera útil para afrontar el futuro y que si hemos estado lastrados por tanta división y por tanto enfrentamiento

a los políticos responsables es barrer la división y el enfrentamiento no la discrepancia la división y el enfrentamiento y buscar puntos de encuentro y el estatuto de autonomía fue un punto de encuentro inédito e histórico

mayor que yo y conoce mucho más la historia seguro de lo que puedo

de verdad y yo entiendo que a ustedes desde la nostalgia les interese más hablar del pasado pero a nosotros nos interesa más hablar del futuro

de la que estamos construyendo hoy aquí no la que tenemos que revisar porque la gente no nos ha elegido

o para que demos cuerda a esta noria vasca que no avanza que se mueve pero no avanza

para que solucionemos problemas y con este tipo de debates no lo solucionamos la gente nos ha elegido para que construyamos una euskadi de futuro en garantías abierto e interconectado y rompiendo puntos de encuentro como es el estatuto de autonomía no estamos en esa dirección y mire

y como construir el futuro de euskadi hay muchas formas pero al menos hay dos

una la que representan el partido nacionalista vasco junto con bildu como colaborador necesario ya no sé quién es colaborador de quién que es una euskadi anclada en los sentimientos particulares en los sentimientos identitarios

setenta y cinco agrupados en grandes grupos pero setenta y cinco porque los sentimientos son imposibles de homogeneizar porque pertenecen a la esfera

y ustedes desde ese anclaje en los sentimientos pretenden construir euskadi

desde las razones compartidas plurales desde el entendimiento político desde las renuncias y que o miramos el futuro

entendiendo por dónde va el mundo entendiendo un mundo cada vez más global lleno de oportunidades en el que todo el mundo se está empeñando en derribar fronteras

y anclada en ideas del siglo diecinueve y ustedes junto con bildu quieren construir una euskadi mirando el retrovisor

y eso ni es bueno para euskadi ni es bueno para los vascos y por eso

y es que ustedes están con el retrovisor buscando qué nos separa nosotros queremos mirar al futuro y buscar lo que une a los vascos y ahí

mire señor egibar dudaba de si siquiera usar el turno de réplica

y además tan absolutamente preocupante e inquietante con lo que ha dicho en esta tribuna que me he visto obligado al final

sabe usted lo que ha pasado entre la mayoría de aquel parlamento y la de este

y las elecciones cambian las mayorías unas veces en un sentido y otras veces en el otro como cuando ustedes la tuvieron y luego la perdieron y eso ni le resta legitimidad ni desde luego tampoco legalidad ni entra dentro

ya no es ni siquiera esta proposición de ley para derogar

acuerdo del anterior ejecutivo del anterior parlamento que ustedes plantean todavía discusiones sobre la legitimidad de aquella decisión y vuelven a decir nosotros solo queremos derogar una imposición pues señor egibar con otra con otra del mismo sentido y sino

en este momento porque no vale decir esta cosa de nosotros respetamos el parlamento solamente pedimos la derogación y ni siquiera décimos

en una decisión autista que no va a consultar con nadie que eso por lo visto para usted es mucho más legítimo y más participativo pero

es que ustedes plantean una especie de teoría sobre la cual

solo se corresponde con la legalidad cuando las decisiones que emanan de este parlamento están o con ustedes en el gobierno o coincidiendo con sus planteamientos y si no es así es una especie de imposición y eso dicho por el portavoz del partido político que sustenta a un gobierno legítimo créame que nos preocupa seriamente

aflora aquí el subconsciente de pensar que este parlamento este gobierno y este autogobierno es una especie de régimen hereditario al que les corresponde a ustedes gobernar en exclusiva

establece muchos factores de inquietud eskerrik asko pastor jauna eztabaida amaituta

muchas gracias señora presidenta señorías

el grupo popular coincide también en la necesidad de clarificar el mapa radiofónico en euskadi clarificar la situación

de adjudicación de licencias de frecuencias de radio modulada porque es preciso

a nuestro juicio volver a realizar de manera inmediata lo más urgente posible

una convocatoria de concurso público que dé seguridad jurídica al sector yo creo que esa seguridad jurídica es necesaria para poder asentar proyectos para poder garantizar inversiones y para poder asegurar efectivamente proyectos de futuro

de la radio en el país vasco es verdad que en la iniciativa que propone bildu se hace referencia

eso suponen acusaciones concretas y además acusaciones graves en relación con el concurso público que sacó adelante el gobierno

cuáles son esas irregularidades a las que hace referencia el proponente que nosotros desconocemos

además de referirnos a esa cuestión sí que

trasladar que para nosotros es fundamental que en cualquier proceso de concurso público de nuevo concurso público de licitación que lleve adelante el gobierno se tiene que respetar los principios

se trabajó también en la legislatura anterior para ordenar el mapa de la radio en frecuencia modulada tratar de defender y de preservar

la libertad de información y de comunicación son principios básicos

defender tratar de defender además la diversidad y el pluralismo en el mapa de la radio en el país vasco tratar de garantizar

entre la ciudadanía y el propio sector que es un concurso abierto transparente y público y desde luego reconocer y proteger también aquellos proyectos de radio que han logrado en el tiempo

proyectos razonables dentro de lo que se pueden considerar proyectos comunitarios o no proyectos

de mayor espectro que han conseguido

reconocimiento también de los ciudadanos nosotros creemos que tenemos ese reto hacerlo además rápido el gobierno yo creo que tiene que tratar de llevar adelante un proceso de concurso que sea

contar y concernir al conjunto del sector de la radio pero tratar de hacerlo además asegurando los principios que venimos reclamando hoy y lo hicimos también ayer en la legislatura anterior los principios que tienen que asegurar un mapa en el país vasco un mapa de la radio que garantice más libertad de información mayor pluralismo

de radio no solo los que ya en una situación de alegalidad ya vienen funcionando sino que otros proyectos que no existen pero se pueden presentar que pueden en este momento

en cualquier parte del país vasco también tengan las mismas oportunidades que los demás para poder presentarse proyectos de nueva creación proyectos que puedan ser liderados

afrontar y desarrollar proyectos de radio en el país vasco creemos que tienen que ser también atendidos y tienen que jugar en las mismas condiciones por eso

que dé igualdad de oportunidades a todos aquellos que quieran presentar y ofrecer un proyecto digno un proyecto que genere puestos de trabajo y el proyecto que genere garantice esos principios de libertad de información de expresión

presidenta de manera breve para decir que nosotros en su momento registramos una enmienda de totalidad que mantenemos y que finalmente si llega el caso votaremos en esa enmienda de totalidad lo que nosotros proponemos es que este parlamento inste al departamento educación a convocar a la mayor brevedad posible un nuevo concurso público para adjudicar las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en frecuencia modulada en euskadi y que sirva obviamente para clarificar la situación de las frecuencias de radio y sirva

la seguridad jurídica proponemos que uno de los criterios fundamentales de valoración a la hora de conceder las licencias sea favorecer la radio de proximidad

la creación de puestos de trabajo y proponemos también que las ofertas presentadas sean analizadas y valoradas por un equipo de técnicos del gobierno y técnicos de empresas y sociedades públicas especialistas en radiodifusión y no por una empresa externa esta es nuestra enmienda de totalidad en todo caso se garantice la pluralidad informativa la diversidad

de información esperamos que este concurso público se convoque cuanto antes y pueda ser obviamente transparente abierto esta es la enmienda que nosotros proponemos efectivamente ha habido un acuerdo mayoritario entre el grupo nacionalistas vascos y eh bildu

legebiltzarkideok egun on guztioi igual que se ha dicho aquí nuestro grupo

la preocupación que se ha expresado sobre las adjudicaciones de licencias de radio de frecuencia modulada y también como ya se ha recalcado

con el interés del gobierno socialista para

licitar y hacer el concurso para la adjudicación de estas licencias como aquí se ha expresado que hubo irregularidades en el proceso antes de entrar en lo que considero que es la resolución del asunto me gustaría comentar algunas cuestiones sobre cómo fue ese proceso porque

o esa aseveración que se ha hecho aquí sobre las irregularidades en el proceso de licitación el gobierno vasco como también se ha comentado

cumpliendo así con el decreto doscientos treinta y uno barra dos mil once sobre comunicación audiovisual

y la complejidad que conllevaba su valoración el proceso estaba pensado para que la adjudicación se hubiera realizado con un margen como mínimo de seis meses antes de que se celebraran las elecciones pero como todos ustedes saben

con una situación que cualquiera de ustedes puede entender además

y concretamente el partido nacionalista vasco instaba a que el gobierno no hiciera ninguna adjudicación por lo tanto a pesar de las características importantes

que se solventaba una situación que no se había movido desde hacía veinticinco años y que se iban a dar licencias para quince años a partir de la adjudicación

que la dimensión de esta licitación tenía un carácter estratégico y que por lo tanto la decisión que se toma

como he dicho antes estaba en una situación de interinidad se toma la decisión de que en razón

del interés general público de esta licitación renunciar a llevar adelante el proceso

de licitación y he dicho renunciar renunciar por

y no desestimar que hubiera sido lo correcto en el caso

irregularidades en el proceso por lo tanto quiero recalcar que hubo una decisión por parte del gobierno en base a los argumentos que he dado a la situación que he descrito la de renuncia y no desestimación del proceso

de estas adjudicaciones de las licencias de radio para frecuencia modulada cuando el gobierno del lehendakari patxi lópez toma esa decisión lo hace con basándose

en todos los informes jurídicos que avalaban esta posición por lo tanto el gobierno toma esa decisión conforme a derecho y porque además

la ley el artículo ciento cincuenta y cinco del la ley de contratos le permite tomar esta decisión

porque además a lo largo de todo el proceso de adjudicación se observaban dificultades a la hora

muchas empresas concursantes la cuestión era desde el punto de vista técnico complejo

que había algún problema se paralizaba el proceso se solicitaban los informes jurídicos correspondientes y hasta que no había una

y un asentamiento jurídico claro no se retomaba el procedimiento de hecho

también de la dirección de desarrollo legislativo en este sentido por lo tanto el gobierno insisto

en base al artículo ciento cincuenta y cinco de la ley de contratos del estado

y se hicieron las correspondientes compensaciones a los candidatos a los licitadores etcétera se publicó en el boletín oficial del país vasco es decir rotundamente se cumplió con todos los requisitos para hacer esta renuncia el portavoz el señor urruzuno el portavoz de bildu

desde nuestro punto de vista no existe un problema existe un problema que hay que adjudicar las licencias pero no existe un problema derivado del procedimiento que se llevó a cabo en la anterior legislatura

estriba en que hay que abrir un proceso rápido claro

y en este sentido es en lo que nosotros décimos que no existe problema que el problema se resuelve simplemente con una licitación con iniciar una licitación por eso no entendemos o nos lo tendrá que explicar mejor cuando dicen que en el plazo de dos meses se resuelva el problema en el plazo de dos meses no yo diría que inmediatamente se inicie un proceso de licitación que es lo que resuelve

en este caso que es que las licencias deben de adjudicarse no existe ningún otro problema y la única forma de resolver este problema insisto es convocando

y eso es lo que abre o da claridad al asunto el resto

como lo van a hacer sin una nueva licitación cómo van a reservar ese problema que dicen ustedes nos lo tendrán que explicar

sobre la base de una preocupación que parece que es común hubiéramos querido llegar a un arreglo o a un acuerdo de transacción con otros grupos pero como no se establece la necesidad de que el proceso de licitación se

de solicitar explicaciones para ver como lo van a resolver y en cualquier caso de no votar a favor de la enmienda de transacción porque consideramos que no ayuda a resolver el problema de fondo
que insisto es el problema de las licencias de fm nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

bi hilabeteko epean erantzuna ematea nosotros no pusimos siquiera enmienda en el sentido de que se traiga porque bueno ya el gobierno está trabajando con ello lo está totalmente

tienen planteado todo el asunto por lo tanto no considerábamos necesario pero no hemos tenido por eso mismo ningún problema en firmar en decir que en el plazo de dos meses se vaya resolviendo la cuestión por lo tanto hemos firmado sin ningún problema pero insisto el gobierno ya está en ello

eta bukatzeko bakarrik señor unzalu yo no voy a entrar por lo menos salvo que vuelva usted al tema en debate con usted ha hecho un esfuerzo tremendo
para justificar que no va a votar está en su derecho pero bueno allá cuidado no tiene ningún recorrido más lo que ha dicho eskerrik asko
arieta araunabeña jauna erantzunen txandan

en el dial están lo que hay que ver exactamente es cómo se regula eso porque aquí han salido

como champiñones radios que han seguido emitiendo desde un ámbito alegal pero han estado emitiendo y llevan muchos años haciéndolo en muchos pueblos y en muchas ciudades del país vasco

ahora hay que ver cómo se regula esto esto es lo importante y esto es de lo que tenemos que hablar porque

su enmienda de transacción lo que dice es

que en dos meses hay que resolver el problema no nos han explicado

de licitación nos está diciendo que en dos meses saca el gobierno el concurso público el señor

araunabeña nos ha dicho aquí que lo que décimos nosotros ni va ni viene pero que ustedes ya están trabajando pero bueno si están trabajando en ello desde hace tiempo nos podría explicar un poco

qué es lo que quieren hacer qué van a hacer ustedes distinto de lo que hicieron

el año pasado qué cosas van a cambiar de aquel concurso qué cosas les parecían mal qué cosas le parecían bien cuál va a ser el procedimiento el planteamiento

ha presentado una enmienda de totalidad diciendo que el euskera esté presente en el mapa de la radio como si no estuviese ya como si fuese a inventar la pólvora firma con bildu

por el arco del triunfo durante todos estos años siempre cualquier tipo de regulación en el ámbito de las radios

para simplemente plantear que ya van a traer ustedes aquí en dos meses algo y que se garantice la presencia del euskera en el ámbito de las radios

en el anterior concurso una reserva específica del treinta por ciento de emisoras para emisoras que emitiesen en euskera bueno pues nos tendrán que explicar ustedes si es que ustedes su planteamiento es elevar ese listón

es que el problema de las licencias de radio no es solo de licitación y de cuando se hace es que detrás de las licencias de radio también hay especulación también hay intereses creados

cuál va a ser el procedimiento público y transparente que quieren llevar adelante para que este sea un concurso que dé seguridad jurídica volvemos a repetirlo

y no solo pensando en dar gusto

libres comunitarias o como las llamen a esa especie de radiobildu que ha poblado euskadi en los últimos años y que desde luego todo menos respetar el pluralismo de nuestro país

o sea con esos van a pactar ustedes su concurso público de radio yo lo que espero es

sirva para todo lo contrario para garantizar mayor libertad

pueda llevarse adelante en el país vasco y si no hagamos un planteamiento liberalizador

claro demos libertad para que todos los proyectos puedan desarrollarse aquellos proyectos viables y que tengan respaldo

y no hipotequemos el futuro de la radio vasca con acuerdos con aquellos que nunca respetaron las reglas

si usted no me explica cómo van a resolver ese supuesto problema que ustedes dicen sin una nuevalicitación tendré que seguir diciendo que no voy apoyar su enmienda de transacción

ustedes no proponen ninguna resolución concreta al problema de fondo insisto el problema de fondo para nosotros es que se adjudiquen las licencias

dicen que se resuelve el problema del concurso público pero si no hay ningún

si cuando el gobierno anterior renuncia se suspende el procedimiento se suspende el proceso por lo tanto cómo vamos a resolver el problema de concurso público si no hay concurso público usted no me dice qué va a hacer

dónde nos va a subir en una alegalidad o qué es lo que hacer si no me lo explica tendré que mantener la postura porque

que como que no queríamos votar sin argumentos no no es que ustedes no nos dan unos argumentos para votar es al revés usted no nos dice cómo

insisto el problema no es el concurso público porque no existe ahora mismo un concurso público el problema es cómo se adjudican las licencias y ustedes aquí

si está reiniciando el proceso de la licitación si está haciendo

no nos dice cómo lo va a hacer señor urruzuno no es una cuestión de dos meses lo que yo lo que le quería decir es lo que le estoy diciendo ahora al señor arieta araunabeña

cómo vamos a resolver esto si no son dos meses si podía ser en uno o en seis no sé en cuantos no es el problema el plazo el problema es administrar el procedimiento que nos lleve a la conclusión que a todos nos interesa que es tener adjudicadas las licencias insisto lo que le he dicho al señor arieta araunabeña

hay que resolver el problema de las licencias el problema de las licencias se resuelve

desde nuestro punto de vista única y exclusivamente con una nueva licitación

el portavoz del pnv muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko

cuantas historias de transparencia no transparencia en fin

resumido y además creo que lo resumo a la perfección nada más señor unzalu me sigue sin decir absolutamente nada usted mismo

yo le estoy diciendo que la situación que dejaron ustedes el tema el gobierno la ha retomado y está trabajando sobre ello para sacar

como debe sacarse nada más cómo la sacará pues ya verá ya veremos pregunte

hoy aquí no hemos venido a debatir sobre lo bueno lo malo o qué bien o mal lo hicieron ustedes que podríamos debatir

si miran ustedes incluso algunos de los que recibieron alguna licencia provisional lo que dicen sobre cómo lo hicieron

pero que vuelvo a insistir que yo no he venido a debatir eso hoy ha habido aquí una propuesta básicamente que se traiga es lo que coincidían todos ustedes y además nosotros hemos dicho sí

por lo tanto por qué quieren buscar otras dificultades les ha molestado que hayamos firmado con bildu está claro por supuesto

señorías no es la primera vez que abordamos en este parlamento este asunto referido a los abusos de las entidades financieras con sus consumidores de hipotecas por las condiciones en las que estas han sido concedidas

hoy el motivo es el índice de referencia de prestamos hipotecarios con anterioridad otros este parlamento hace unas semanas por mayoría amplía acordaba instar al gobierno de españa y a las entidades financieras a realizar en el menor plazo posible las modificaciones normativas necesarias

a los consumidores que fuera completo y suficiente este parlamento pedía una regulación lo más clara posible sobre los criterios

para considerar como abusivas las cláusulas de la hipoteca y además señalaba que teniendo en cuenta la sentencia emitida por el tribunal de justicia europeo

sobre las denominadas cláusulas suelo se procediera de oficio a eliminar de los contratos de hipoteca las cláusulas suelo y demás cláusulas abusivas además y en esa misma sesión este parlamento mostraba su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la necesidad de modificar

en la legislación española por oponerse a la sentencia emitida por el tribunal de justicia de la unión europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos así como la necesidad de adecuar la legislación a la sentencia del tribunal supremo relativa a esas denominadas cláusulas suelo

algo ha pasado para que hoy volvamos a estar aquí y lo que ha pasado es que nada ha cambiado luego no es la reiteración del asunto lo que destaca y nos trae

es la persistencia del problema es el daño que está causando a las economías más necesitadas

por el abuso económico y social que el gobierno de españa y las entidades financieras que están abusando están amparando y ejerciendo

la orden de transparencia y protección del cliente entre otras cuestiones esta orden prevé la desaparición de los índices de referencia de prestamos

por un nuevo índice análogo de prestamos hipotecarios a más de tres años

de españa la completa desaparición de los citados índices se debía producir transcurrido un año de la entrada en vigor de la orden y su normativa de desarrollo siempre que en ese plazo se hubiera establecido el correspondiente régimen de transición

ha pasado el año y también dos meses más y todavía no tenemos regulación y nos lo fían

es evidente que la aprobación del régimen transitorio podría suponer un alivio para muchas familias que cada día ven cómo la evolución a la baja de referencia interbancaria

no tiene impacto en el pago de su deuda pendiente al aplicársele un índice de referencia ya extinto

sí podría tener un efecto beneficioso sobre su renta disponible alivio que se hace más necesario si se tiene en cuenta la situación de quienes adquirieron vivienda de promoción pública de protección o similares y aquellas que están próximas a una situación de insolvencia pero la realidad manda y el gobierno de españa lo que nos dice es que a fecha de hoy no está dispuesto a utilizar los recursos que tiene a su disposición para legislar y evitar

el retraso en la aprobación del régimen transitorio está permitiendo que los contratos firmados no incorporen una alternativa a la desaparición de los índices de referencia de prestamos

por las entidades financieras para negociar con los prestatarios el cambio de prestamos sin garantías de información y de protección suficiente para esos afectados es evidente que si se hubiera acordado un régimen transitorio referenciado al euribor se habría conseguido

para muchas personas que sufren las consecuencias de la crisis económica estamos ante una grave dejación de funciones del gobierno de españa

insolidaria y antisocial señorías hoy hablamos del precio que hay que pagar por los créditos hipotecarios de viviendas o lo que es lo mismo hablamos de cientos de miles

del país vasco hoy hablamos de un producto financiero más de los muchos que existen de esos que se pueden definir entre otras maneras

y peligrosos donde a pesar de que las condiciones de evolución del precio del dinero y de su repercusión

el vacío normativo la falta de iniciativa del gobierno de españa la postura intransigente de cajas y bancos está llevando a que los tomadores de los créditos no encuentren ese relativo beneficio ya que quienes tenemos sensibilidad social podremos convenir

por una vivienda con valor de especulación y con salario devaluado o rebajado pueda tener un respiro en esta enorme carga económica llegados a este punto está claro que hablamos una vez más de la desigual relación

ciudadanía por un lado y con el sistema financiero por otro

ni el banco de españa están reaccionando socialmente y no será porque no han tenido tiempo porque no se les ha pedido que lo hagan porque el problema humano no sea visible o porque no se hayan facilitado propuestas y soluciones efectivamente

lo peor nos tememos que esta demora para actuar

que es más margen para las entidades financieras para que ejerzan su fuerza y presión y renegocien en su beneficio bajo el pretexto de que no hay otra alternativa

solo quiere darnos lo peor somos y seremos incansables en nuestro empeño de hacer justicia social donde solo hay abuso y exceso

en estos últimos años en un sistema dependiente patrocinado y financiado por el dinero público y por el dinero privado de las economías sencillas

una acción que atisbe algún gramo de sensibilidad social también es tremendo que el gobierno de españa una vez más por enésima vez en tiempo récord acumule un nuevo agravio y desencuentro con una parte importante de la ciudadanía a quien dice gobernar que además

la que más dificultades pasa y por lo tanto la que más necesita de la política

señorías detrás de los contratos hipotecarios con cláusula suelo hay abuso especulación ocultación en la información fíjense hasta qué punto esto es un escándalo

el tribunal supremo varios juzgados mercantiles juzgados de lo contencioso administrativo así como organismos y

de defensa del consumidor un escándalo que se ilustra con hipotecas concedidas en muchos casos a la carrera de la lectura de un notario con imposibilidad de ser digerido su contenido por el receptor y con lo que es peor

de que en esas circunstancias era posible abusar de la confianza por desconocimiento de quien siempre es el eslabón más débil en el proceso de adquisición de una hipoteca

cláusula nula también hay sentencias que piden la devolución del dinero obtenido

del dinero obtenido los intereses y el pago de las costas del proceso incluso hay sentencias como en el caso visto en el juzgado de lo contencioso administrativo

a una cláusula suelo techo donde se sentencia que la sanción está bien impuesta ante el abuso

pero sí podemos y debemos pararlos y corregirlos por si el asunto pudiera tener alguna gracia se puede afirmar que estamos ante un producto hipotecario que no es ilegal que todavía hoy sigue vigente y que además es indefendible y porque es indefendible porque es un exceso más de los muchos que hay porque es indigno en una sociedad democrática

es por lo que la política debe intervenir en ayuda al interés general de la ciudadanía y en ayuda al interés social de una sociedad que quiera ser decente

porque cuando un problema particular individual familiar se convierte en problema colectivo la política tiene la responsabilidad de resolver protegiendo a esa ciudadanía en vez de añadir un castigo más como es el de tener que hacer un peregrinaje a los tribunales de justicia

por cierto una justicia que este gobierno también pretende evitar dificultando su acceso gratuito como todo el mundo sabe los derechos de la ciudadanía valen

si las garantías no se pueden ejercer por un problema económico los derechos podrán quedar a merced de quienes menos escrúpulos tengan que a estas fechas están

señorías la política que se hace desde la sensibilidad social y en defensa del interés general debe ayudar a tantos cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que

se ahorrarían cantidades que van desde los cien euros hasta los cuatrocientos euros mensuales

anuales el tribunal supremo ha apreciado hasta seis formulaciones abusivas en algunos de los créditos en estos últimos cinco años hemos pasado

de un euribor del cinco coma cuatro por ciento en el dos mil ocho a un dos coma nueve en dos mil once y a cero coma cincuenta y cuatro en bi mila hamairu y sigue bajando

que han creado una situación de injusticia tremenda para los intereses económicos y sociales de demasiadas personas que esa parte del sistema financiero que ha hecho

ese agujero a la economía pública jugando irresponsablemente con la especulación financiera con la especulación inmobiliaria también pueda jugar con la economía doméstica

para capitalizarse además tenga más apoyo activo y pasivo por el gobierno de españa que el conjunto de la ciudadanía no es de recibo

instituciones en estos días se suceden iniciativas similares a estas iniciativas en las que los socialistas queremos

establezca ya el régimen transitorio que sustituya la cláusula suelo por un precio del crédito hipotecario referenciado como se señala en el euribor los socialistas queremos

a las economías desequilibradas por un coste de crédito excesivo en sí mismo

si se relaciona con la capacidad de los recursos que se tienen desde las rentas del trabajo por eso se propone transitoriamente de euribor más el uno por ciento un tipo de interés que como se ha demostrado no destroza el sistema financiero

establecido incluso proponemos que se recurra a la forma legislativa más rápida posible para que esta situación se corrija ya está es la intención y la propuesta socialista

un encuentro un acuerdo con el grupo nacionalista que se ha hecho mediante enmienda transaccional que se ha aportado a todos ustedes y que espero cuente también
con su apoyo muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

desde las cláusulas suelo procedimiento hipotecario toda esa legislación que venía de los gobiernos socialistas y que el gobierno del pp es el que las está cambiando

si no le importa a usted me voy a centrar en lo que usted hoy nos ha traído que es ni más ni menos

la orden del gobierno de españa del veintiocho de octubre de dos mil once del ministerio de economía de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios lo cual deduzco deduzco que dado que usted nos pide

del gobierno de españa del partido popular y al parecer a usted lo que le molesta

que tiene esa sensibilidad social de la que alardea aquí cada vez que interviene

se le adelante en más de un año haciendo esa orden y además aplicándola y ejecutándola y por lo tanto

que una medida del gobierno de españa le parece tan buena que lo que hay que hacer es acelerar su ejecución y su cumplimiento antes incluso de las fechas previstas por la propia medida cosa que en fin se le había olvidado por lo visto hacerlo al gobierno anterior esto de cambiar los tipos de referencia y por lo tanto yo

y estoy de acuerdo en parte con lo que usted está proponiendo y digo en parte porque usted comete algunos errores en su iniciativa

que es que el gobierno no ha establecido el régimen transitorio basta con que usted

para ver que solo tiene una disposición transitoria y que evidentemente está fijado ahí el régimen transitorio que es el euribor

sigue siendo el euribor por lo tanto sí hay régimen transitorio y además supongo que usted sabe

aprobó la circular cinco barra dos mil doce en ejecución

lo que no entiendo es por qué dice usted que las hipotecas son productos tóxicos y peligrosos hasta ahora no le podrán gustar más o menos pero en fin los que tenemos hipoteca nunca nos molestará pagar más pero en fin de ahí a calificarlas productos

pues no lo entendemos mucho y yo de esta iniciativa soy ya quizás con tanta sensibilidad social

alguien que recoge todas las sensibilidades sociales de la calle y no se preocupa en saber

que se pretende trasladar aquí una idea que es más o menos la siguiente poco más o menos usted nos está diciendo que es el ministerio de economía el que fija los tipos de interés

usted sabe que eso no es cierto y todos los que estamos aquí sabemos que eso no es cierto incluso si alguien tiene alguna duda

digamos más repetidas de los ciudadanos en esta materia es si los bancos o las cajas tienen obligación de fijar un tipo de interés a la hora de dar unas hipotecas y evidentemente es no como no podía ser de otra forma otra cosa

fijen tipos de referencia en su momento usted se acordará del mibor el mibor fue sustituido por el euribor y eso significa que no se publique todos los meses por el banco de españa no por qué porque todas las hipotecas anteriores al euribor que fijaban

evidentemente siguen pagando conforme al tipo de interés que se pactó que estaba

no dejó de serlo pero es obligación evidentemente del banco de españa para que los consumidores sepan cuál es ese tipo referencia a cuanto está

cierto peligro que usted nos venga aquí a plantear poco más o menos que como no se fijan nuevos tipos oficiales la gente pierde dinero

a nadie le va a cambiar el tipo que tiene fijado y pactado en su hipoteca los nuevos tipos oficiales servirán de referencia para las nuevas hipotecas que se hagan a partir de esa fecha eso lo sabemos todos ahora sí le tengo que dar la razón en una cosa es decir el gobierno sí que puede modificar algunos tipos de interés

anuales para prestamos convenidos sobre viviendas de protección oficial cosa que el gobierno del partido popular y por eso supongo que está usted molesto con el señor guindos

que tiene más sensibilidad social que usted ya lo hizo en marzo pasado y bajaron

de los planes de vivienda desde mil novecientos noventa y dos hasta el dos mil ocho porque eso sí depende del gobierno de españa y eso se hizo en el mes de marzo por cierto sin que nadie le instara al gobierno de españa a hacerlo ni aquí

que usted nos dice hoy que quiere que se ejecute y se cumpla antes de lo previsto en la propia orden pero en cualquier caso yo lo que le tengo que decir es que los problemas que tengan con kutxabank no sé que problemas tienen con kutxabank el pnv y el partido socialista consejeros tienen ustedes en el banco

los tipos de las hipotecas que tiene oiga plantéenlo el consejo de administración de kutxabank no es el ministerio el que le puede decir a kutxabank cuál es el tipo de interés que tiene que cobrar a la gente lo hace kutxabank

que si el ministerio tiene que fijar los tipos de kutxabank con nada parecido o confundir un tipo de referencia como ponen en el número dos de la enmienda transaccional que han firmado ustedes decir que tiene que ser el euribor más un punto oiga el euribor más un punto o más dos o más cero coma cinco o más cero coma siete

a la hora de fijar cuál es el prestamo el tipo de prestamo que da a cada cliente el tipo de referencia es el euribor no es el euribor más uno por qué tenemos

tipo de referencia que es absurdo poner el más uno y por qué el más uno

porque kutxabank tiene como segundo tipo este hay otras entidades que lo tienen más bajo o

esta sensibilidad social parece que a la hora de fijar cuál debería de ser el tipo que tienen que pagar los que tienen hipotecas con kutxabank oiga bájenlo plantéenlo en el consejo de administración de kutxabank hay entidades bancarias y financieras

pero no es el ministerio de economía el que tiene que fijar

a cambiar los índices que tienen por otros pero si igual son peores los segundos índices de referencia que pueden tener por qué considera usted que son mejores los que tienen todas las entidades financieras y bancarias a lo mejor el segundo que tienen de referencia es peor para el que tiene que pagar el prestamo que el primero pero en cualquier caso lo que le repito es que

nos alegramos mucho y estamos de acuerdo con usted en que queremos que se ejecute

en octubre de este año y como tampoco tenemos ninguna duda de que el que originó la orden el que creó la orden el que aprobó la orden la va a cumplir su propia orden y la va a ejecutar pues nosotros evidentemente también le instamos al ministerio

que es lo que viene previsto en la propia orden que usted quiere que se ejecute eskerrik asko

baina ondo eginda indize hauek konpontzeko el veintinueve de octubre del dos mil once

lo que nos trae aquí hoy de esta orden tiene que ver con su artículo veintisiete que desarrolla los tipos de interés oficiales existentes ya unificados a nivel europeo

se prestan dinero unos a otros y la disposición transitoria única que establece un régimen transitorio para el resto de los índices o tipos de referencia que van a desaparecer

es el caso de los índices de referencia de prestamos hipotecarios de cajas y bancos por ejemplo

que estos índices desaparecerán al año de entrada en vigor de la ley

desaparecerán al veintinueve de abril del dos mil trece siempre y cuando

el correspondiente régimen de transición para los prestamos afectados y como no ha habido régimen de transición estos índices o tipos de interés que tenían que desaparecer siguen vigentes da igual que los prestamos tengan un índice alternativo en sus cláusulas o no

tampoco preveía que el régimen transitorio solo es para los que no tienen índices alternativos porque si los tienes no necesitas un régimen transitorio

por lo tanto hay dos problemas que están sin resolver el primer problema generado por el gobierno de españa gobernado por el partido popular que no ha sido capaz de hacer en un año y medio un régimen transitorio para aquellos prestamos que no tienen un índice alternativo

veamos el asunto porque rajoy toma posesión el veinte de diciembre del dos mil once

no ha sido capaz de hacer en un año y medio un régimen transitorio para aquellos prestamos que no tienen un índice alternativo

por el gobierno de españa pero cuando gobernaba el partido socialista porque cuando se publicó la ley el veintinueve de octubre del dos mil once

no fue capaz de recoger en esa orden un artículo

los apliquen directamente cuando caduquen al año los índices o tipos antiguos como es el caso de estos índices de referencia de prestamos hipotecarios de cajas y bancos por ejemplo por lo tanto

los prestamos en cuyo clausurado hay un índice sustitutorio y cuándo se aplica y los que no lo tienen y qué índice aplicamos

la diferencia entre los tipos de interés oficiales existentes casos del euribor y los tipos de interés a desaparecer como índices de referencia de prestamos hipotecarios de

un índice vigente como el euribor más uno en abril del dos mil trece está

y los índices de referencia de los prestamos hipotecarios de cajas y bancos que tienen que desaparecer en abril también del dos mil trece

estaría solucionado el problema haciendo un régimen transitorio que dé solución a los prestamos en cuyo clausurado hay un índice sustitutorio y cuándo se aplica

ya sería suficiente el resto de nuestros puntos ya son un todo por si acaso no son capaces de hacer este gobierno el primero

el punto tres es para que no se olviden de que hay prestamos con índices alternativos que se pueden aplicar ya directamente y el punto cuatro es ya cuando ya todo está perdido y la administración pública ya es incapaz de hacer nada

y avance buscando un equilibrio entre la grave situación económica

y las entidades bancarias de ahí nuestras aportaciones para que este tema avance y no se enquiste porque en año y medio ya hemos visto que no se ha hecho nada de nada

ese régimen transitorio que permita la desaparición de los índices antiguos y dé solución a los prestamos en cuyo clausurado hay un índice sustitutorio y cuándo se aplica
y los que no lo tienen qué índice aplicamos estaría solucionado eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

sí gracias presidenta obviamente votaremos a favor de la enmienda de transacción que han firmado el grupo socialistas vascos y el grupo nacionalistas estábamos de acuerdo con la iniciativa

esta transaccional es básicamente la original por lo tanto votaremos a favor de ella nos parece una iniciativa justa y necesaria previamente y antes que nada cabe denunciar otra vez un nuevo engaño y un nuevo abuso el engaño que sufrieron miles y miles de hipotecados por parte de bancos y cajas

irph como un índice más seguro y estable que el euribor sin otro objetivo que hacer caja sin otro objetivo que vender hipotecas más rentables obviamente para sus cuentas tenemos el caso de las preferentes tenemos el caso de las aportaciones financieras subordinadas

tenemos la gestión infame de las cajas de ahorros por parte de representantes de los partidos políticos tenemos su rescate con dinero público y ahora tenemos determinados índices aplicables a los prestamos hipotecarios

y miles de ciudadanos engañados y perjudicados víctimas de los abusos de las entidades financieras y de un gobierno de españa

que no da soluciones sino que crea y agrava esos problemas o que al menos ralentiza la implantación de determinadas soluciones cientos

a sufrir de forma especialmente virulenta la crisis económica el paro

los impagos y desahucios víctimas por lo tanto no solo de una crisis económica descomunal sino también víctimas de un poder político que la agrava que no la hace frente y que no toma las decisiones que debe tomar

de seiscientos euros que pagar una cuota mensual de novecientos euros

por poner dos simples ejemplos por lo tanto miles de ciudadanos perjudicados por esta serie de decisiones o no decisiones tomadas

por los diferentes gobiernos de españa que hemos padecido durante los últimos tiempos en dos mil once se decidió que el irph dejara de ser objeto de publicación mensual

y se fijó un plazo de un año para su desaparición completa con todos sus efectos para ello era necesario que en ese plazo

se hubiese establecido el correspondiente régimen transitorio

cosa que aún sorprendentemente no ha ocurrido dado que el actual gobierno dice en respuesta a una pregunta planteada por upyd

está en fase de estudio la definición del régimen de transición dieciséis meses después año y medio después casi y sin tomar el gobierno de españa esta

desconocidas muchos hipotecados sintieron es verdad un pequeño alivio cuando conocieron la noticia de que el banco de españa y el gobierno de españa anunciaban la desaparición del irph caja y del irph bancos

sin embargo hay otros muchos hipotecados que tienen señalado como sustituto del índice desaparecido el índice entidades que no desaparece y cuyo cálculo todavía se desconoce otros dependen de decisiones que no dependen de ellos y mientras se ven

a la inoperancia la opacidad y la lentitud del gobierno de españa que sigue sin proceder a la eliminación del irph cajas irph

del régimen transitorio cosa que obviamente aprovechan las entidades financieras para seguir haciendo caja a costa de los ciudadanos insisto dieciséis meses ha tenido el gobierno para aprobar el régimen transitorio y sorprendentemente y por razones digamos que desconocidas no lo ha hecho insisto mientras tanto miles y miles de ciudadanos que claman al cielo y piden justicia

que íbamos a apoyar la iniciativa original apoyaremos finalmente esta transaccional estamos de acuerdo con cada uno de los cuatro puntos que se plantean nos parecen absolutamente justos y necesarios para dar una solución justa a estos miles de ciudadanos perjudicados por los abusos

de los últimos gobiernos de españa y en concreto del último gobierno de españa gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza